lo cierto es que me llevé una profunda decepción cuando leí el denominado acuerdo que suscriben los partidos políticos eaj pnv y

psoe para conseguir una euskadi más moderna solidaria y sostenible y competitiva el pasado día dieciséis de septiembre

señor consejero leí el documento con un espíritu constructivo el país necesita acuerdos y los acuerdos necesitan contenidos reales

económicas y sociales que tenemos este documento

olvido económico y social la economía social y con la que está cayendo

se hace especialmente clamoroso y entiendo que debe de ser subsanado vía actuación gubernamental en el desarrollo de ese acuerdo vía nueva redacción del mismo acuerdo o ampliarlo con algún anexo más ya tiene algunos o vía parlamento o

que pueda dar este parlamento en relación con ese error de concepto y de análisis

en cualquier caso a ese profundo olvido ni cuando en el acuerdo se habla de impulso a la economía productiva y a la creación de empleo ni cuando se habla de sostenimiento de nuestra modelo social de servicios públicos en lo concerniente al acuerdo para la reactivación económica

aparece el término de economía social y un desarrollo sobre qué bases se va a trabajar para el fomento para la visibilidad de esta forma tan importante tan nuestra de la economía señor consejero salvo en lo estrictamente

mención a las cooperativas que no a la económica social en su conjunto esta forma básica esta forma social de producción económica y de generación de empleo desaparece

se olvida en ese acuerdo su señoría cuando expuso en la comisión de empleo y políticas sociales los objetivos las propuestas de su departamento para la décimo legislatura señaló lo siguiente se lo voy a recordar porque estuvo bien impulso de la económica social con ayudas

de economía social y dotación de herramientas de gestión para ellas

el documento firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista también decía usted difusión y es muy importante y usted señaló

el hecho de que la economía social desaparezca de un documento de un acuerdo que supuestamente tiene que ser tractor de nuestra economía que tiene que ser importante menuda forma de difusión

estructuras asociativas pero bueno consolidación de la economía social

no es necesario en un acuerdo de alcance para el conjunto de la economía como es este

impulso consolidación y difusión de la economía social ejes de sus iniciales propuestas de gobierno que desaparecen de los contenidos expresos de un acuerdo que va a ser el que seguramente o prácticamente va a sustentar que el país este año y en los años próximos

la introducción del acuerdo bases para acuerdos de país en beneficio de la ciudadanía vasca que nos permitan salir de la crisis crear empleo y avanzar hacia una sociedad más cohesionada solidaria

global una visión de conjunto sí señor consejero pero con un gran olvido

esta interpelación señor consejero es eminentemente constructiva yo quiero criticar el olvido pero sobre todo quiero llamar la atención sobre el mismo para que ese olvido no se materialice en la práctica no se materialice en la actuación del gobierno

de los acuerdos y de los contenidos de este acuerdo cooperativas sociedades laborales empresas de inserción centros especiales de empleo las nuevas empresas pft de las que tanto se habla y usted lo habla

cofradías de pescadores sociedades cooperativas pequeñas sociedades agrarias de transformación

que sí que tenemos que hablar del papel económico que muchas fundaciones y muchas asociaciones de utilidad pública o no llevan consigo en el aspecto económico bueno eso es el concepto de economía social eso es lo que no aparece en ese acuerdo y del que le reclamamos haya algún tipo de rectificación por lo menos vía de hecho

como factor propio de interés específico y declarado en ese documento que han firmado los partidos políticos y que debe de desarrollar y que debe de servir de pauta

señor consejero subsanen el error porque una mínima mención al mantenimiento de los tipos fiscales de las cooperativas cuestión de la que habría mucho que hablar y mucho que actualizar

no es hablar del conjunto de la economía social ni siquiera es hablar de la fiscalidad de la economía social además de sus objetivos para la economía social que antes he expuesto que usted declaraba el lehendakari

un nuevo proyecto de ley de cooperativas para el dos mil catorce también tenemos pendiente una comunicación del gobierno sobre economía social a instancias de este parlamento ahora más necesaria que nunca después de la constatación

en épocas anteriores y después de que sea confeccionada definitivamente lo que creo estará haciendo en este momento el gobierno es decir a la importancia teórica

su plasmación en el acuerdo y lo quiero reseñar para que no se produzca ese olvido de hecho en la actuación del gobierno

con medidas que tendrán que materializar señor consejero la primera visita oficial del lehendakari

a un centro especial de empleo es decir fue a una empresa de economía social pues todo eso o ese esfuerzo teórico

ha desaparecido del acuerdo y no puede ser así nosotros llamamos la atención sobre esa cuestión y queremos interpelar

las medidas los criterios del ejecutivo que va a llevar a cabo el gobierno vasco para superar esos olvidos para superar los déficits que se identifican en el acuerdo del dieciséis de septiembre en lo relativo a la economía social

que formará parte de la acción del gobierno y por ello nosotros consideramos necesario

consejero describa cuál va a ser la conducta gubernamental en hacer que las políticas de reactivación económica

conecten de verdad con las necesidades del sector de la economía social muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi agradezco señor barrio antes de nada

de verdad creo que tiene un tono constructivo pero permítame alguna matización no entiendo su decepción cuando se dice y usted lo ha recalcado que este país está necesitado de acuerdos

todo acuerdo puede ser ampliado pero los acuerdos en todo caso sientan las bases de la colaboración y si de algo estamos necesitados

mire tampoco en el acuerdo se hace referencia por ejemplo a la dignidad de las personas usted cree de verdad que se podría decir

yo sinceramente creo que no y ha hecho referencia en varias ocasiones a que desaparece del acuerdo y del acuerdo no desaparece en todo caso no aparece en el acuerdo porque si desaparece parecería que hubiera existido

y ha hablado también de un esfuerzo teórico y estético refiriéndose a la primera visita del lehendakari a un centro especial de empleo yo le garantizo que el compromiso de este del lehendakari y de su gobierno con las empresas de economía social es un compromiso práctico mejorable seguramente pero práctico mantiene en su interpelación el señor carmelo barrio que el acuerdo que

y partido socialista para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva

tiene entre otros un olvido clamoroso hacia la economía social nos gustaría recordar algo que

y es que efectivamente estamos hablando de un acuerdo entre grupos políticos

por tanto entendemos que lógicamente quizás el señor barrio

porque este gobierno no forma parte de ese acuerdo más allá de su condición de canalizador de las acciones

también y dicho con toda humildad señor barrio recordarle

se sumó al mencionado acuerdo a primeros de octubre aunque bien es verdad que únicamente en el ámbito fiscal y no a la totalidad del mismo

para esa adhesión su partido planteó esta cuestión que entiendo que les resulta de importancia pero creo que hubiera sido bien acogida seguramente por dos razones porque creo que la mayoría y a pesar del enorme problema

reconocemos el valor presente y el valor de futuro de la economía social en euskadi

jurídicas de organización de una empresa implique una exclusión o un olvido tampoco se habla de la empresa mercantil y no creemos que haya un olvido en tal sentido dice el señor barrio que han sido muchas las alusiones políticas del sector doctrinales y académicas

esa preocupación del señor barrio y le garantizo le garantizo que comparto los criterios de la economía social

aparezcan en la economía social como el principal valor a preservar

se debe procurar una configuración de las entidades que integran la economía social fundamentalmente para su reconocimiento en la interlocución con los poderes públicos

para el desarrollo de políticas de promoción y estímulo de las entidades que componen la economía social sin ir más lejos la semana pasada estuvimos

en la entrega del premio txemi cantera y el pasado sábado tuve ocasión de compartir con varios de los parlamentarios y parlamentarias de esta cámara

donde toda la economía social estaba presente en señal del apoyo

de este gobierno a la economía social la comunidad autónoma tiene título competencial por la forma jurídica sobre algunas de las entidades de la economía social que usted ha enumerado y que voy a obviar

pero no sobre todas ellas podemos legislar sobre algunas de las materias y no sobre otras los objetivos que se señalan a los poderes públicos

para la promoción y la difusión de la economía social se han puesto en práctica y se vana seguir actualizando

no es nuevo el impulso que este gobierno le está dando a la economía social como bien hemos reiterado en determinados foros y como usted mismo ha reconocido poniendo

en el anexo uno del mencionado acuerdo se habla de la reactivación de la economía y el empleo

y crear empleo perdón tiene que ser prioritario al objeto de aportar soluciones a los más

dentro de estos parámetros entendemos se encuentra también la economía social ya que al igual que no se menciona expresamente la economía social como le decía tampoco se hace alusión alguna a las empresas mercantiles ni a otro tipo de economía específica por lo que entendemos que esa palabra del concierto de economía tienen cabida todo tipo de empresas y en eso

en desarrollar los conceptos que aparecen en ese acuerdo entendiendo además que el movimiento cooperativo

un siete por ciento el acuerdo recoge que el empleo no es una variable independiente que

y de factores internos relacionados con la competitividad de las empresas la

políticas todas ellas que el gobierno debe incentivar a través de una estrategia global de reactivación económica y de empleo sobre la base de los presupuestos ordinarios de actuación esta situación de emergencia exige una actuación conjunta del gobierno diputaciones forales y ayuntamientos y demanda también la contribución económica de los fondos estatales y europeos orientados a la creación de empleo

y a la generación de empleo el acuerdo contempla compromisos y ejes de actuación

el plan plurianual a favor de la reactivación económica y del empleo al que se alude

e iniciativas de actuación medidas a favor de la inversión y la innovación también en el ámbito de la economía social

y medidas a favor del emprendimiento y la economía local también

de la economía social en ninguna de las mencionadas medidas que recoge el acuerdo se especifica ningún tipo de forma jurídica por lo tanto entendemos que la economía social está recogida

además se pondrá en marcha un programa específico de prestamos dirigidos a trabajadores y trabajadoras de las empresas de menos de veinticinco trabajadores para facilitar su participación en el capital de la empresa y en otro párrafo se dice establecimiento de un fondo euskadi para facilitar prestamos con el objeto de la toma de participaciones privadas

en el capital de iniciativas empresariales y dentro del programa de participación de los trabajadores en las empresas entendemos por lo tanto señor barrio

manifiesta cuando se refiere a que existen lagunas en el acuerdo

entendemos que con una interpretación de la palabra economía en un sentido amplio abarcando tanto la economía social como la mercantil podemos trabajar y eso creo que es

del fomento de la economía social y nos gustaría volver a recalcar señor barrio que estamos hablando realmente de un acuerdo entre partidos políticos no de un acuerdo de gobierno no obstante como entiendo que la economía o es social o no es economía

sobre el impulso de este gobierno con la economía social muchas gracias eskerrik asko aburto jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta gracias también al consejero por sus explicaciones
efectivamente se constata que de economía social

aunque puede haber una filosofía mire las palabras son importantes

definitivos para propiciar la reactivación económica los conceptos definen actitudes y

es más que una forma jurídica economía social es mucho más algunos

es una filosofía de emprendimiento o de actuación laboral económica

es una forma social es una forma económica de entender la productividad el trabajo el empleo el desarrollo económico la innovación es más es más que una denominación señor consejero y eso no sale en el acuerdo ese acuerdo

claro que sí lo ha tratado de hacer una interpretación extensiva entender que todo está recogido pero no es verdad y usted sabe que no es verdad porque usted entiende lo que es la economía social y lo sabe hay muchos que no lo entienden

porque hay que dedicarle atención y además ustedes han dicho que la van a difundir que la van a consolidar que la van a fomentar eso hay que hacerlo también es un instrumento de trabajo yo sé

entre grupos políticos pero usted mismo ha dicho usted va a ser el canalizador de otros departamentos de la batuta del lehendakari de ese acuerdo político y eso es así por eso mismo yo soy constructivo en relación

a que no se olvide de lo que se ha olvidado el documento es decir a que lo visibilice a que lo ponga negro sobre blanco de verdad en la actuación del gobierno

instrumentos en otras declaraciones internacionales mundiales es decir es que la economía social hay que entenderla bien mire acuerdos

se ha creado en la onu un grupo de trabajo interinstitucional las naciones unidas sobre economía social y solidaria

en cuál están las claves de la onu pues ahí están tendiendo superadores de la crisis el parlamento europeo

importante resolución de julio de dos mil trece también hace muy poco sobre el papel de las cooperativas y el conjunto de la economía social en la salida de la crisis hace poco hace pocos días en septiembre de dos mil trece la comisión europea

para los países del mediterráneo con medidas específicas de fomento de la economía social o sea hay que decirlo señor consejero hay que decirlo en los acuerdos o en los documentos importantes que buscan la reactivación económica y del empleo hay que decirlo y hay que hablar de economía social quiero reseñar lo que decía el propio parlamento europeo

que las cooperativas junto a todas las empresas de economía social desempeñan un papel esencial en la economía europea

con la solidaridad crear puestos de trabajo de calidad reforzar la cohesión social

generar capital social reconoce asimismo que las empresas de la economía social debieran contar con un marco

que tenga debidamente en cuenta la gran diversidad existente entre las entidades de la economía social así como sus características específicas hacía una declaración una resolución

que las claves en las que se va a mover el grupo de trabajo interinstitucional

que el documento que la comisión europea ha aprobado en relación con la cooperación

el fomento de la economía social son cuestiones importantes el propio parlamento vasco aprobó en

esenciales que se debieran de trasladar al día a día a documentos como este que han firmado el partido socialista y partido nacionalista vasco y que se ha olvidado

señor consejero se me acaba el tiempo nosotros con una moción ayudaremos al gobierno

muchas gracias eskerri asko barrio jauna

sacarle de ese empecinamiento sobre el olvido pero insisto en que

es un concepto extraordinariamente amplio en el cual yo le garantizo que este consejero

afinidad especial con la economía social y le diría más con la economía solidaria y que entiendo que

recursos y allí donde se esté jugando algo la economía social no tenga ninguna duda de que este gobierno va a estar presente porque como usted decía las palabras son importantes pero como alguien también decía por sus hechos les conoceréis y yo lo que quiero es que nos juzguen

por cuál es nuestra implicación real con la economía social le voy a poner algunos ejemplos porque realmente este gobierno mantiene

un programa de economía social mantiene una dirección de economía social y en el presupuesto en el proyecto de presupuestos para el año dos mil catorce

seguramente usted me dirá que no es suficiente y yo le diré que hasta a mí también me hubiera gustado seguramente que fuera mayor pero el dato objetivo está ahí un seis coma seis por ciento de crecimiento mire difusión y fomento usted ha señalado varias veces el acuerdo con asle como una parte de esa economía social asociaciones

pero es que estamos a punto de firmar otro acuerdo con confecoop con el movimiento cooperativo que englobe a todo el movimiento cooperativo

cuantos foros y jornadas se han desarrollado en este país a lo largo de este último año en el ámbito de la economía social

hemos promovido a lo largo de estos meses ocho júnior cooperativas

pequeño pero que ha servido para poner en marcha ocho cooperativas por emprendedores jóvenes en el presupuesto de este año está prevista la creación de la estrategia vasca de la responsabilidad social empresarial están previstos también en

dotaciones para ayudas para la incorporación de socios al social de las cooperativas también las propias ayudas para algo muy importante en el ámbito de la economía social como son las propias estructuras asociativas para el fomento de reas de la red de economía alternativa y solidaria para el fomento de para el fomento de asle de confecoop

ayudas a la propia constitución de cooperativas y de sociedades anónimas laborales hoy en algunos puntos anteriores hablábamos de la destrucción de empresas podemos poner encima de la mesa datos también positivos de que este año se llevan constituidas la ayuda de la dirección de economía social ciento ochenta cooperativas y esperamos que el año que viene puedan ser más tenemos también y aparecen

colaboración con los tres viveros de empresas saiolan

colaboración con entidades educativas que puedan impartir formación técnica relacionada con futuros proyectos

en el ámbito de la economía social en el ámbito cooperativo en el ámbito de las fundaciones en el ámbito de los centros especiales de empleo no le voy a insistir señor barrio en que ese es un acuerdo en el que por cierto estoy seguro que si

desde el partido popular se hubiera instado el que apareciera un párrafo en ese sentido no hubiera habido el más mínimo problema sino que se hubiera arbitrado lo procedente

naturalidad porque el compromiso de este país el compromiso del partido al que represento y el compromiso de este gobierno con la economía social creo que es claro y notorio

el lehendakari del gobierno vasco y usted señor gatzagaetxebarria en su calidad de consejero

son válidos y adecuados para reactivar nuestra economía y crear empleo sin embargo más allá de esas declaraciones lo que vemos en las comparecencias que los consejeros han

imprescindible por otra parte para reactivar la economía y que se recorta la misma cantidad

la previsión del gobierno establece una nueva pérdida de puestos de trabajo de

y la contundencia del golpe de las consecuencias derivadas también

un consumo privado que difícilmente va a tener conclusiones positivas si lo que vemos son una depreciación de las pensiones una pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía en general a través de la bajada de salarios

que las propias previsiones de los países a los que se pretende exportar por ejemplo alemania están revisándose a la baja

es adecuado para reactivar la economía eskerrik asko

un recorte del uno coma nueve por ciento del gasto público son dos conceptos distintos usted se basa en el escenario macroeconómico

catorce que es una caída de consumo público que tiene uno coma nueve por ciento el consumo público es un concepto económico indistinto del gasto público el gasto público aumenta un nueve coma dos por ciento

el gasto público del presupuesto aumentaría seis coma dos el concepto consumo público abarca tres vertebrales de la economía por un lado lo que es el gasto en materia de pago a los asalariados públicos en segundo lugar las amortizaciones derivadas del conjunto de actuaciones o de inversiones que tenemos que hay que

toda la compra de bienes y servicios que se realizan en la sociedad es decir lo que se llaman los gasto de funcionamiento fundamentalmente hay un dato importante en ese aspecto de gasto público que es el contrato programa como

la mitad señor matute de lo que es los presupuestos de la comunidad autónoma está configurado

empleados públicos que dependen del presupuesto del gobierno vasco y luego los grandes gastos de funcionamiento que suponen una partida importantísima en los presupuestos para el próximo

de consumo y gasto público son distintos el consumo público es un indicador que se utiliza tanto en las estadísticas económicas como en las previsiones económicas pero que es en economía un concepto distinto que del gasto el gasto ya le digo que es el nueve coma dos por ciento le vamos a quitar el efecto

hay un incremento del gasto público el gasto público que va dirigido fundamentalmente a dos objetivos en los presupuestos mantener el modelo vasco de protección social por un lado en sus tres grandes áreas sanidad educación y lucha contra la exclusión social y en segundo políticas dirigidas a reactivar también la economía mediante

y también en el área del empleo y la innovación y en la investigación que son herramientas importantes para lograr la modernización de nuestro tejido económico sustentado en un modelo de desarrollo sostenible y fundamentado en el conocimiento en la formación

porque yo no llego a las mismas conclusiones probablemente porque tengamos dos modelos diferentes porque ustedes seguramente cuando piensan en reactivar la economía están pensando en reproducir la generación de beneficios es decir la reproducción del capital y nosotros donde ponemos el acento es en la sostenibilidad de la vida de la economía al servicio de la sostenibilidad de la vida creo que son dos factores probablemente

una valoración diferente porque cómo sino se entiende que pese a sus esfuerzos que yo no voy a poner en duda una de cada cuatro familias pasen dificultades severas para llegar a fin de mes el veinticuatro coma dos por ciento de nuestra sociedad está pasando dificultades severas para llegar a fin de mes hay un doce coma dos por ciento que ha aumentado en dos años seis puntos que tiene dificultades más que severas para llegar a fin de mes es decir directamente no llevan a fin de mes y tienen que echar mano de ingresos extras o adicionales

hay más de la mitad de los desempleados que no cobran prestación por desempleo alguna y esa cifra va a aumentar porque probablemente las prestaciones por desempleo que están cobrando también desaparecerán en la medida que cumplan el tiempo máximo fijado para el cobro de esas percepciones

lo que vemos que usted nos habla de protección social pues lo que es a todas luces evidente señor gatzagaetxebarria es que la protección social es insuficiente

la misma cuantía elevando los requisitos para acceder a las mismas

fuera de los umbrales de protección social por tanto es una economía con una perspectiva muy poco humana o humanista que le gusta decir en su partido en cualquier caso ya lo decía el señor

eso es lo que está pasando también aquí en la comunidad autónoma vasca porque se sigue una doctrina de la austeridad que fía todo

a las ayudas a las empresas pero en cualquier caso lo que vemos es que avanzamos hacía una sociedad menos igualitaria

y desde luego sí que creemos que hay que actuar y creemos que hay que actuar de manera decidida creemos que hace falta un plan de emergencia para el empleo de calidad un sistema financiero o la defensa de un sistema financiero público a través de kutxabank o una progresividad fiscal y la soberanía fiscal pero sobre todo y fundamentalmente

una intervención decidida y dejar la actitud procrastinadora que está teniendo este gobierno a través de la intervención en el sector público

que los marcos legales impiden determinadas cuestiones yo solamente citaré el artículo once punto dos del estatuto de autonomía tan venerado en esta cámara que dice en su apartado b que la reserva al sector público de recursos
o servicios esenciales y la intervención de empresas cuando lo estime el interés general matute jauna denbora amaitu zaizu

gracias señora presidenta señor matute mire le voy a poner dos ejemplos el compromiso con las personas que tiene como el frontispicio de la gestión de este gobierno en segundo lugar un modelo de desarrollo económico

un crecimiento inteligente es la preparación de las personas en segundo lugar un crecimiento integrador qué es un crecimiento integrador un crecimiento integrador es un crecimiento que soporta

y sobre todo un crecimiento sostenible que dejemos a las siguientes generaciones capacidad para que puedan hacer sus propias políticas cuando les corresponda

euskadi es una comunidad autónoma pionera en fomentar un sistema alternativo y complementario al régimen general de la seguridad social muy a la seguridad social el sistema público de garantía de ingresos que protege en este momento a noviembre de dos mil trece a sesenta mil personas que por diferentes segmentos necesitan de recursos

le digo el treinta y nueve por ciento de la ayuda en renta de garantía de ingreso en materia de cohesión social

y en sanidad en educación porque tenemos una escuela social
concertada y una escuela pública y el conjunto nos lleva a ser pioneros en el gasto per capita nada más eskerrik asko

muchas gracias presidenta señorías señora consejera la constitución española establece que los poderes públicos tendrán

y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones garantizando el derecho que asiste a los padres y madres

con sus propias convicciones en el acuerdo entre el estado español y la santa sede sobre enseñanza y asuntos culturales se reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y además se han suscrito pactos internacionales que garantizan ese ejercicio el ejercicio de este derecho

no tendrá carácter obligatorio así lo dicen las leyes nuestro ordenamiento no tendrá carácter obligatorio para los alumnos pero sí que se garantizará sin embargo el derecho a recibirla de quien lo reclame para la aplicación real y efectiva de estos derechos los poderes públicos deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos así como la formación religiosa en los centros docentes públicos por eso hoy le interpelamos como ve

lo hemos traído en otras ocasiones hoy volvemos a llamar la atención aquí en esta cámara sobre esta preocupación algo que

pero que esperamos que por fin esta vez pueda usted tener la sensibilidad suficiente como para atender como le decía esta preocupación y solucionemos

esta cuestión usted señora consejera el pasado mes de marzo coincidiendo con el inicio de la matrícula del curso participó

organizado por las diócesis vascas allí se encontró usted también con muchos profesores de religión de la escuela pública vasca un simposio que trataba sobre las contribuciones educativas de la clase de religión usted participó en él y allí

que la sociedad vasca es una sociedad plural y que su gobierno muestra respeto por conocer todas las posiciones sobre la educación que la sociedad vasca es rica lo que permite un profundo respeto a todos y a todas y que ese respeto el respeto es la clave de la convivencia usted decía la base para construir

mejor usted además mostró una buena disposición con respecto a lo que allí se planteaba y públicamente dijo que atendería desde esa buena disposición

aparecieron declaraciones suyas públicas y en otras publicaciones realizadas por los organizadores

que fuera diligente aplicando la sentencia del tribunal constitucional allí se lo dijeron públicamente

en la aplicación de la sentencia del tribunal supremo sobre el bachillerato la sentencia de agosto del dos mil doce que como usted muy bien conoce trata de solucionar de una vez por todas los problemas que se están produciendo en el tratamiento de la asignatura de religión en el bachillerato

este mismo año en el mes de marzo yo le pregunté en nombre del grupo popular por escrito si tenía constancia de la existencia de una campaña para condicionar

en las enseñanzas de religión en los centros públicos de la comunidad autónoma vasca usted me respondió diciendo

textualmente me dijo no tenemos constancia de la existencia de ninguna campaña de esas características no sé si lo recuerda usted pero venía firmada

por usted queremos preguntarle si hoy se reafirma en esa misma respuesta es curioso

esa campaña tuvo reflejo hasta en los medios de comunicación públicos carteles en centros públicos cartas dirigidas a los padres denuncias que

por parte de las diócesis vascas me gustaría que en estas cosas

nuestro grupo que sobre estas cuestiones nos pareciesemos más a los países de nuestro entorno en todos los países o en casi todos los países de la unión europea

problema alguno esto es un hecho que hemos tratado de exponer aquí en otras ocasiones en alemania

en finlandia en grecia en holanda en irlanda italia noruega polonia portugal reino unido suecia suiza incluso

laica francia en todas ellas en todos esos países que les relato en todos esos países de europa se estudia con carácter obligatorio

en otros se ofrece la capacidad

pero con una asignatura alternativa a la religión en todo caso lo cierto es que en europa las clases de religión son una norma habitual y se imparten en centros de todo tipo

normalidad por eso nos preguntamos y le preguntamos desde aquí hoy a usted por qué esto es cada vez más difícil aquí en el país vasco

con una sentencia firme para que se aplique la ley para que la asignatura de religión se pueda empezar a impartir con normalidad en el bachillerato porque hasta aquí hemos tenido que llegar por qué pues

creo que le puedo asegurar lo hemos hecho otras veces pero le puedo asegurar hoy aquí después de esas respuestas parlamentarias que en el país vasco

y usted lo conoce hoy creo que le podemos asegurar desde esta tribuna que en la comunidad autónoma vasca sí existe una campaña

yo se las puedo acercar a su escaño una campaña por parte de asociaciones y colectivos

a la hora de matricular a sus hijos en las enseñanzas de religión en los centros públicos de la comunidad autónoma existe esa campaña y podemos afirmar más

no se está cumpliendo que esas asociaciones que dirigen esas campañas reciben dinero público dinero de su departamento acaso desconoce que hay grupos escolares hoy

se van a su casa en lugar de cursar la obligatoria asignatura alternativa a la religión que se da a elegir o te quedas a la clase de religión o te marchas a tu casa o en algunos casos

o si optas por no estudiar religión tienes la posibilidad de que se te dé refuerzo en matemáticas incluso refuerzo en inglés esa es la disyuntiva que hoy tienen muchas familias decidir si quieren optar por la religión o no para sus hijos lo que está ocurriendo es que en muchos centros públicos

esa asignatura como usted sabe que debería sustituir a la religión no se le está diciendo a las familias oiga usted puede elegir religión

esa que se llama debida atención educativa y que usted tiene la responsabilidad de arbitrar de acuerdo con los centros educativos en qué consiste no

otra cosa por eso hoy nosotros queremos preguntarle qué piensa hacer al respecto qué piensa hacer para cumplir esa sentencia del tribunal supremo para hacer

es decir creemos que la sentencia del tribunal supremo es muy clara que la ley es clara

esta alternativa llamada debida atención educativa ustedes lo saben bien usted sabe que esto no se está cumpliendo no porque se lo diga yo ahora sino porque conocen perfectamente

y desde luego nosotros creemos que la opción por una escuela pública laica es legítima

pero no podemos olvidar que la apuesta educativa debe estar orientada hacia una educación integral también lo hemos reclamado aquí en otras ocasiones

un desarrollo de todas las dimensiones de la persona también de la dimensión trascendente o religiosa por eso creemos que usted tiene una responsabilidad no puede mirar para otro lado y tiene que dar una respuesta concreta ya

lehendakaria legebiltzarkideok egun on señor oyarzabal el propósito del departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco es el de garantizar el derecho de las familias a que sus hijos e hijas

este fin se llevará a cabo desde el máximo respeto y cumplimiento del principio de igualdad por ello este gobierno aboga por un sistema educativo no confesional basado en criterios de objetividad tolerancia y neutralidad que garantice la libertad de elección de las personas y la no discriminación

el decreto ciento setenta y cinco barra dos mil siete de dieciséis de octubre

sigue manteniendo que los alumnos y alumnas mayores de edad o sus padres madres o tutores legales manifestarán al inicio de curso su voluntad de recibir o no las enseñanzas de religión

los centros docentes deberán disponer las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa a quienes hayan optado por no cursar las enseñanzas de religión

no podrá suponer discriminación alguna solo se podrá optar por el aprendizaje de contenidos curriculares correspondientes a otras materias cuando se garantice que esta circunstancia

en lo que respecta a la enseñanza de la religión en el bachillerato el tratamiento de la misma ha variado como consecuencia de la aplicación de la sentencia del veinte de julio de dos mil doce del tribunal supremo

azaldu genuen según los datos de matriculación del curso actual mil ochocientos sesenta alumnos y alumnas de bachiller han optado por estudiar religión mientras que cuatro mil novecientos cincuenta y dos se han decantado por cursar

cabe señalar que tan solo cuatro alumnos han solicitado estudiar otras religiones por lo que no ha sido posible formar el grupo mínimo exigido para poder atender dichas peticiones

además de la adecuación del proceso de prematriculación se ha llevado a cabo la necesaria modificación de las instrucciones para la elaboración de calendarios y horarios en ellas se indica que el horario mínimo de primero y segundo de bachillerato

por tanto se aumenta una hora destinada a religión o a alternativa así mismo se ha modificado la resolución de la viceconsejera de educación y del viceconsejero de formación profesional y aprendizaje permanente

y en los institutos de formación profesional para adecuarla a la nueva situación por último el pasado veinticuatro de octubre de dos mil trece

la modificación del decreto por el que se establece el currículo de bachillerato en los términos exigidos por la sentencia antes referida aurretik esan dudan bezala

edukien irakaskuntza barne hartuko a fin de guiar a los centros educativos

de la alternativa para el curso dos mil trece dos mil catorce este departamento remitió con fecha de tres de julio de dos mil trece un escrito de la viceconsejera de educación

como entidades representativas de los centros privados concertados junto con el escrito se remitieron un total de cinco propuestas para la alternativa que se puede ofrecer al alumnado que no cursa la materia de religión

contenidos y orientaciones de las mismas y se hacía especial hincapié en los siguientes aspectos la oferta

la elección de una u otra opción no debe suponer ninguna discriminación

deberá adaptar las sugerencias realizadas a su contexto y a su proyecto educativo la alternativa podrá ser impartida por profesorado de cualquier departamento

y se trata de seleccionar contenidos que resulten de interés para el alumnado

en definitiva señor oyarzabal el departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco ha dado todos los pasos necesarios para garantizar

a que sus hijos e hijas reciban la debida formación religiosa siempre desde el máximo respeto al principio de igualdad y sin que esta circunstancia pueda suponer discriminación alguna

muchas gracias señora presidenta señora consejera usted viene aquí a decirme que asume todos los planteamientos sobre el papel

pero nos habla de posición neutral

la neutralidad no puede suponer mirar para otro lado la neutralidad no puede suponer permanecer impasible cuando usted conoce perfectamente que hay grupos que están ejerciendo presión y coacción a las familias en muchos municipios del país vasco

para acondicionar la elección en relación con la asignatura de religión yo creo que usted no se ha aplicado el cuento no se ha aplicado de verdad con determinación en hacer efectiva esa sentencia usted

hasta el tres de julio del dos mil trece en plena semana de matriculación con la que estaba cayendo muchos meses después de ser elegida y habiendo asistido a denuncias de colectivos de profesores y también aquí en esta cámara de que se estaban produciendo esas campañas esperó hasta el tres de julio

donde se les informaba de la determinación que habían tomado de cara a acatar la sentencia del tribunal supremo un año después

alternativa educativa de atención educativa esa alternativa a la religión pero sin embargo la viceconsejera de educación conocía perfectamente desde el principio de curso

todos los casos cada uno de los casos donde el alumno que no ha elegido la religión

la asignatura alternativa incluso se estaban yendo a sus casas lo conoce su departamento

a su casa fuera del horario escolar si imparte la religión o se les dice

sigue con su hijo en religión va a perder horas de inglés va a perder refuerzo en matemáticas qué han hecho ustedes al respecto

usted ha esperado nada más y nada menos que hasta el veinticuatro de octubre veinticuatro de octubre de este año de dos mil trece para publicar en el boletín oficial del país vasco el decreto que acata

hasta el veinticuatro de octubre de este año para un decreto de cuatro páginas han sido necesarios quince meses para un decreto de cuatro páginas

de brujas en muchos centros de nuestra comunidad a nosotros desde luego no nos parece razonable creemos que hoy

usted puede garantizar que esto que le estoy contando no ocurre usted me puede garantizar que esto ya no ocurre en

donde se han expresado protestas y quejas en relación con la coacción a las familias en un mismo centro escolar donde se están produciendo circunstancias dobles donde a algunos chicos se les manda a casa y a otros se les imparte asignatura de refuerzo

cuando se aumentan las horas lectivas de las materias troncales a los chicos que no eligen religión y se produce también una discriminación a nuestro juicio

debe ser obligatoria y de elección voluntaria y sin embargo esto no se cumple en muchos casos especialmente en gipuzkoa

los grupos directivos de los centros se están ocupando de comunicar a las familias desde la ventanilla del propio centro o por vía telefónica que en su centro escolar nadie puede apuntarse a las enseñanzas de religión puesto que así lo ha decidido el claustro se le avisa a los padres se comunica a las familias que el claustro ha decidido que en ese centro no se ofrece religión

autonomía del centro así lo han decidido los propios profesores o la asociación de padres que en muchos casos es beligerante en contra

sin ir más lejos en el centro de salburua en la ikastola umandi en

centros en los que ha habido denuncias de padres y usted me dice que permanece neutral ante una campaña para sacar la religión de los centros creemos que desde luego

de hacer más en las condiciones en las que nos ha expuesto la situación desde luego me extraña que incluso haya mil ochocientos familias que hayan decidido que sus hijos opten por la religión en este caso hay que dar una batalla y hay que ser heroico para mantener

harremanetan jarri gara hainbat aldiz egokitze prozesua ahalik eta ondoren egiteko este departamento ha mantenido contactos periódicos con la diócesis

la ultima reunión tuvo lugar el pasado veintidós de octubre en dicha reunión se trataron diferentes asuntos sobre la manera más eficaz de realizar la prematricula y la matrícula para que nada impida el ejercicio del derecho a la enseñanza de religión

también se informó sobre las actuaciones realizadas con respecto a la alternativa desde el mes de mayo y se estableció un inspector en cada uno de los territorios

así mismo este departamento tiene firme compromiso de intervenir en cualquier caso de incumplimiento que se detecte como siempre ha hecho no he dicho en ningún momento

al respecto le diré que por el momento se ha materializado una única intervención de la inspección de educación

y se ha solicitado que se corrija esta situación hemos puesto las medidas y en los casos que hemos tenido ocasión y constancia hemos intervenido y en cuanto a los plazos de cumplimiento señor oyarzabal debe usted saber que este departamento ha cumplido con su compromiso

sin embargo existe aún un asunto pendiente cuya resolución no está precisamente en nuestras manos debe saber que este departamento de educación política lingüística y cultura ha solicitado a los representantes diocesanos de los tres obispados el currículo de la religión católica para el bachillerato puesto que a día de hoy y tras casi cuatro años trascurridos desde la publicación del decreto curricular

como usted bien sabe señor oyarzabal dicho contenido curricular es de su competencia y debe ser publicado en el boletín oficial del país vasco en iguales condiciones que el resto de las demás disciplinas fundamentales y esperamos que esta carencia pueda ser subsanada a la mayor brevedad
en cuestión de cumplimientos yo creo que hay todavía quien va peor que nosotros eskerrik asko

gracias señora presidenta señora uriarte señores

no tiene director o directora por la decisión de e i te be de que esta histórica emisora sea dirigida desde bilbao

etcétera concluiremos con que el proceso de reorganización y reducción del ente público empieza

dimensionada menos desmesurada de la institución radio televisiva que es la radio

ya podemos atisbar que el declive en la programación en las horas propias de emisión

radiofónica se verán seriamente afectadas a la baja en un futuro inmediato con lo que vitorianos y alaveses perderán calidad informativa en su radio pública más cercana

existencia pero parece ser que negros nubarrones

le alcanzan por eso mismo nosotros queremos clarificar esta cuestión

y las garantías de desarrollar una labor profesional informativa ejemplar como

años tan ligada a la vida vitoriana a la vida alavesa y a sus vecinos y por eso nosotros preguntamos a la señora consejera en relación con las decisiones que hayan ido tomando

con qué criterio a trabajado e i te be para entender que una radio territorial con la trayectoria arraigo e importancia como medio público en álava de radio vitoria deba ser dirigida desde bilbao

señor barrio para su tranquilidad y la de toda la ciudadanía le diré que radio vitoria seguirá trabajando para los vecinos y vecinas de vitoria gasteiz y de álava

reorganización y posibles cambios de radio vitoria sin embargo debe quedar perfectamente claro que radio vitoria es y seguirá siendo una de las cinco emisoras del grupo e i te be

porque la dirección de e i te be opera como un grupo de comunicación multimedia multicanal que cuenta con varias sedes beraz eitb taldeak

eitb barne hasta ahora el grupo de radios de e i te be contaba con un total de tres directores y un coordinador como consecuencia del redimensionamiento se ha pasado a contar con un único director y un subdirector para las cinco radios del grupo

así como con el personal de redacción y todo el personal necesario para ofrecer un servicio público de calidad

garantizamos la calidad del servicio ofrecido por radio vitora manteniendo los recursos y las condiciones necesarias para ello

dirigía desde aquí desde la propia radio vitoria nosotros notamos que al gobierno vasco no le preocupa mucho radio vitoria

hubo que aprobar una proposición no de ley en esta cámara contra el criterio del partido nacionalista vasco me da la sensación de que

del nuevo gobierno hay una desafección del ente público con la radio alavesa que vuelvo a decir que el año que viene cumplirá ochenta años de existencia ligada a la realidad vitoriana y alavesa

del ente público radio televisión vasca de e i te be

donde se ha instalado el ente público e i te be

del presupuesto de e i te be y es una radio líder en vitoria en muchas franjas horarias

su origen jurídico como sistema de radiodifusión vasco

irratia el parlamento vasco decía aprobó el pasado junio una clarificadora

se atenga al criterio y a la actuación de

propuestas por la dirección de e i te be puesto que ponen en peligro la calidad de la programación de radio vitoria o suponen una importante

el tema de la dirección de radio vitoria es un tema que se liga a esta exigencia que le hace el parlamento vasco me da la impresión de que es una mala idea

radio vitoria se dirija desde bilbao no es una radio de bilbao es una radio vasca de vitoria y desde aquí se debiera de dirigir desde el día a día de la emisora aquí en vitoria y para todos los vitorianos y para todos los alaveses piénselo bien muchas gracias

radio vitoria es una de las cinco emisoras del grupo e i te be y constituye una parte relevante de su oferta

zein garrantzitsua den radio vitoria guretzat insisto somos consciente de la trayectoria arraigo y singularidad de radio vitoria

gestionada desde vitoria gasteiz mantendrá todo el personal necesario para ofrecer el servicio de calidad que la ciudadanía de vitoria y de álava merece y como no podía ser de otro modo contará para ello con el apoyo los recursos y las sinergias propias del modelo diferenciado del grupo e i te be

gracias presidenta buenos días señora consejera

a día de hoy el euskera en euskadi es obligatorio para casi todo

poder ser miembro del gobierno para poder ser consejero o para poder ser

prácticamente para todo lo demás es indispensable saber euskera sobre todo en lo que se refiere al acceso

lo cierto por lo tanto es que el euskera ya es obligatorio también para acceder a muchos concursos públicos de la administración el próximo paso pueden ser las subvenciones a las empresas lo cierto es que el documento general del plan de acción para la promoción del euskera

la propuesta de exigir determinadas condiciones lingüísticas a las empresas que pretendieran acceder a subvenciones de la administración vasca en su tramitación parlamentaria

esa propuesta del plan fue eliminada fue supuestamente

gracias a una enmienda de upyd gracias a una propuesta de resolución de upyd que fue apoyada por varios partidos de la oposición y la abstención

esa propuesta de upyd fue votada de manera favorable tanto por upyd evidentemente como por el partido popular y el partido socialista de euskadi y tanto eh bildu como el partido nacionalista vasco se abstuvieron upyd después de aquel debate

a usted sobre determinados aspectos de aplicación del plan en una de ellas relacionada con esa aplicación en el mundo de la empresa la consejera contestaba textualmente que el establecimiento de criterios lingüísticos no está reñido en sí mismo con el respeto al principio de igualdad de oportunidades principios que siempre han sido y serán respetados por el gobierno

efectivamente realizamos varias preguntas en relación al establecimiento de criterios lingüísticos a la hora de otorgar subvenciones a asociaciones y empresas

la utilización de instalaciones públicas y garantizar que se cumplen los requisitos lingüísticos además de preguntas

que iban en esa línea la respuesta dada por el gobierno nos genera por lo tanto importantes dudas sobre la voluntad del gobierno de respetar la voluntad del parlamento

impositivos para las empresas en sus relaciones con la administración pública y en el acceso a subvenciones dudas sobre la voluntad del gobierno de no incidir

de oportunidades por lo tanto le preguntamos si va a respetar el gobierno la voluntad del parlamento en el sentido de no exigir condiciones lingüísticas a las empresas que soliciten subvenciones al gobierno es decir para que no se rompa
de igualdad gracias eskerrik asko

hala ere egia da beste ebazpen batzuk ere egon zirela eta bozkatu zirela a propuesta del grupo popular se presentó y aprobó la siguiente resolución

insta al gobierno vasco a no establecer criterios lingüísticos a la hora de conceder subvenciones y ayudas públicas que supongan una ruptura del principio de igualdad de oportunidades

de hecho y en cumplimiento del esep ratificado por el parlamento vasco

también en materia de concesión de subvenciones así como las posibles líneas de ayuda del área socioeconómica eskerrik asko

sí gracias presidenta evidentemente no vamos a repetir aquí el debate que hubo en aquella comisión el plan se debatió y cada grupo pudo exponer sus planteamientos yo realizaba una pregunta concreta en relación a la posible discriminación o en relación al principio de igualdad

va a romper este principio de igualdad o no y en concreto si va a respetar lo que el parlamento aprobó en esa concreta el acuerdo y el consenso están bien pero evidentemente hay que ver el contenido y nosotros lo que le pedimos y le exigimos es que descarte condicionar

si esto se va a respetar o no eskerrik asko

es nuestra voluntad y deber velar por el cumplimiento de la legalidad vigente incluida la relativa a la protección de los derechos lingüísticos de la ciudadanía

y como no puede ser de otra manera se va a respetar lo aprobado en el parlamento eskerrik asko uriarte andrea

este artículo debe entenderse en el sentido de que el plazo que se fija el treinta y uno de diciembre de dos mil trece lo es para que los funcionarios afectados

en las instituciones sanitarias de titularidad pública

o dependientes a cada uno de los servicios de salud y efectivamente se integren o bien para que opten por permanecer en activo

en este último caso la comunidad adscribirá a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas conforme

puedan articularse por ella pudiendo establecer en estas bases que la adscripción se realizará cuando existan plazas vacantes guzti honek

en las apreciaciones sobre el real decreto dieciséis barra dos mil doce

creo que voy a coincidir con usted en que vamos a intentar que las personas afectadas que en el caso que me pregunta son los médicos generales

de los servicios sanitarios locales en el caso de euskadi

y a una edad próxima a su finalización de prestación de servicios en la administración pública pues vamos a intentar

ningún problema para continuar haciendo sus funciones de la misma forma lugar salario etcétera que hasta la fecha

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones en el artículo diez vino a modificar el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud aprobado por ley

regulando la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas en el régimen del personal estatutario de los servicios de salud

concretamente en el primer trimestre desde el departamento de salud trasladamos

de adaptar dicha disposición para lo cual la dirección de recursos humanos del ente público ha venido trabajando en una propuesta para ofrecer la integración del personal funcional sanitario de carrera en las instituciones sanitarias públicas

estatutario como bien ha dicho usted el citado real decreto establecía un plazo que finaliza

dentro de unos días y contempla como bien le he dicho médicos generales practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten su servicio en los servicios de salud y por extensión

aquellos que tengan una reserva de puesto de trabajo por causas establecidas en la legislación vigente y también es extensivo al personal en situación de excedencia

el plazo previsto en la legislación reguladora de su situación para solicitar el regreso al servicio activo y siempre y cuando con anterioridad a la declaración de excedencia se encontraba prestando servicio en las organizaciones de servicios actualmente dependientes

osakidetza que entiendo que es lo que le interesa siguiendo las indicaciones del departamento de salud

sindical para su discusión en la próxima mesa sectorial que está convocada la semana próxima

discusión con los sindicatos la propuesta que les vamos a hacer la propuesta que les vamos a hacer y que es la que hemos trabajado corresponde a la dirección general de osakidetza la resolución quien convocará un proceso de integración

y vamos a mantener que quien se quiera integrar como personal estatutario se integre y vamos a articular los medios para quien quiera mantenerse como personal funcionario en el mismo sitio

aquellas personas aquellos profesionales que opten por la integración adquirirán la condición de personal estatutario fijo del ente público

la propuesta que hemos elaborado y que pasará la discusión por la mesa

por la integración los efectos de la misma y el procedimiento a desarrollar el borrador elaborado

para intentar que no tenga una segunda vuelta y

pues el personal que voluntariamente no quede integrado

le vamos a exigir que tenga que participar en el primer proceso de movilidad que a tal fin

porque va a quedar así en la propuesta y en la resolución del director general que garantizaremos que va a tener un plazo de cadencia de cuatro ofertas públicas de empleo

que por la edad que tienen garantizando el plazo de cuatro ofertas públicas de empleo

y los derechos de las personas que voluntariamente quieran pasar a personal estatutario o que quieran quedarse

se ha trabajado para intentar que no tengan problemas y también le reconozco a usted que

dentro de mes y medio pues también yo pensaría creo que tiene usted razón en que probablemente

pero bueno así han sido las cosas no tengo la cifra exacta de trabajadores a los que les afecta en el conjunto de los veinticinco mil ochocientos treinta y dos personas que es la que plantilla estructural de osakidetza es un volumen

se lo enviaré cuál es el personal que les afecta había una mesa sectorial si yo no estoy confundido

próximo jueves y dada la importancia de algunos temas que iban a la mesa sectorial como eran el plan de ordenación de

el plan de euskera entre otros pues se ha estado valorando hasta ayer la posibilidad de partir la mesa y hacer dos no sé si en días continuos

pero desde luego la previsión es que era para el jueves y si no será la semana siguiente con seguridad me ha preguntado por el personal laboral espero no confundirme creo que no le afecta creo que afecta al personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas y solo al personal funcionario a los que se les exige el paso

y luego desde que tuvimos conocimiento del problema porque esto

de tratamiento por parte del grupo parlamentario en el congreso de los diputados o en el ministerio nuestra

ha sido no modificar la situación de las personas que voluntariamente no quisieran porque entendíamos

en euskadi con este tema entonces no abordar problemas que no tenemos yo tengo en la mano la resolución que les vamos a presentar como borrador

pero le he resumido a usted los puntos claves y están tal como se los he relatado nuestra voluntad es negociarla con ellos

los aspectos claves que es voluntariedad plazo incertidumbre y mantenimiento tanto de condiciones salariales

van a ser así con lo cual entiendo que no debiera haber grandes dificultades

la negociación no tengo tampoco ningún inconveniente en si la mesa se celebra el jueves

lo reconoce pero se remite a la ley general y en el ejercicio de su capacidad de autogobierno en materia de consumo ni va a realizar un informe sobre el incumplimiento de la legalidad ni va a aplicar sanciones es llamativo que renuncie a un esfuerzo en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias

y es llamativo porque la ausencia de medidas de este tipo deja a los clientes en el limbo hablamos de este teléfono al que hay que llamar para informar de los datos del contador de la luz

o de una atención para el suministro del gas del teléfono para resolver problemas con el servicio telefónico o para dar parte al seguro de un siniestro que precisa de atención urgente

y por el que le vuelven a cobrar cuando hace uso del mismo

de consumo que sanciona estas malas prácticas al punto que incluso hay una empresa eléctrica

de atención de forma gratuita en esa comunidad mientras que lo cobra en el resto de españa también en euskadi y el último gobierno socialista en españa en dos mil once aprobó un proyecto de ley de servicios de atención al cliente

aunque no prosperó por la disolución de las cortes el gobierno de rajoy tiene intención distinta

sino obligar a que las empresas cuenten con un teléfono cuyo coste no sea superior al de la tarifa básica con estos datos le preguntamos cuál es el criterio del gobierno vasco en relación a la posibilidad de que kontsumobide actúe en la defensa de los consumidores vascos

por no contar con números gratuitos de atención al cliente eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

sarasua andrea bueno quiero empezar diciendo claramente que

siempre ha actuado y va a actuar en defensa de las personas consumidoras en euskadi kontsumobidek

me reitero en que respetamos la normativa general de protección a las personas consumidoras así como cada una de las normativas sectoriales que recogen obligaciones para las empresas respeto a proporcionar números gratuitos de atención

de este departamento y de kontsumobide es claro en materia de defensa respecto a los números de tarificación especial en el caso

reclamaciones o denuncias repito

por el incumplimiento de la legalidad se procederá a la comprobación del hecho y se procederá siempre a la apertura del correspondiente expediente sancionador

le pedimos que kontsumobide no solo sea un receptor de quejas sea muchas o pocas sino que sea un instrumento activo de defensa de los derechos si usted

para analizar esos incumplimientos y establecer las sanciones pertinentes pues como ha hecho cataluña lo menos que se espera es que se muestre

ya le he dicho que hay otra regulación en marcha que ni siquiera prejuzgamos le preguntamos a usted si en su condición de consejero responsable de consumo a través de kontsumobide va a realizar alguna propuesta que mejore la protección de los consumidores le preguntamos

si tiene interés ni siquiera sabemos cuánto se está cobrando realmente por estas llamadas le pedimos que informen a los usuarios a que en tanto en cuanto no se logre modificar la actitud de estas empresas

según sea lo mejor para el usuario porque los ciudadanos desconocen que este tipo de llamadas están excluidas de las tarifas planas cada vez más frecuentes y ya puestos le pedimos que cambie el número novecientos dos que figura

y sea sustituido por un número gratuito o de tarificación ordinaria porque los ciudadanos suelen solicitar esa cita a través de los teléfonos de sus ambulatorios pero

le pedimos en definitiva que cuando se constata un problema como usted constata no se limite a echar balones fuera que haga algo para paliarlo

le agradezco suficiente la propuesta sobre osakidetza una vez más

pero bueno bienvenida sean las áreas de mejora

a la pregunta que me ha hecho le diré aproximadamente señora sarasua veinte personas veinte

han realizado consultas en las oficinas de kontsumobide sobre el tema que me pregunta usted y además le aclaro hemos recibido veinte consultas ninguna reclamación veinte consultas ninguna reclamación

es en este contexto de desigualdad donde debemos enmarcar las agresiones

algunos factores como la constante sexualización de las niñas la imagen del cuerpo de la mujer como mero objeto de deseo el estereotipo de

incontrolable que lo exime de la responsabilidad de sus actos o la naturalización del acoso como estrategia de acercamiento sexual

que sufren las mujeres jóvenes y que por ser sutiles los asumimos como normales

beti ere neskak estigmatizatu gabe edo jarrera arriskutsuen erantzule egin gabe es fundamental una educación afectivo sexual que facilite que las y los jóvenes desarrollen una sexualidad basada en el respeto y la igualdad es necesario dirigirse especialmente a ellos subrayándoles el papel que deben jugar para prevenir todo tipo de agresiones y la adopción de un papel de responsabilidad sobre sus propias

al mismo tiempo invitamos a la ciudadanía y de manera muy especial a los y las jóvenes a participar activamente

en los diferentes actos que se lleven a cabo con motivo del día veinticinco de noviembre

así como en el programa de prevención y educación para la igualdad entre la juventud beldurbarik